a la sociedad y al conjunto de los agentes económicos el mensaje adecuado con respecto al fondo de inversión público privado que el gobierno ha anunciado que va a poner en marcha un mensaje adecuado porque hoy a través del acuerdo

con claridad se va hablar con rigor se va hablar con definición

elementos que hasta ahora han brillado por su ausencia y por tanto aportar todo esto en relación a este fondo es el mensaje de credibilidad que necesita el gobierno para poner en marcha una operación

en los que se define el acuerdo al que hoy hemos llegado cuenta con el respaldo de eh bildu porque en el fondo de lo que se trata es de invertir

en las empresas industriales de este país para aumentar su arraigo y mejorar su gestión un planteamiento con el cual desde la izquierda no se puede sino de acuerdo y también mandamos no solo ese mensaje de claridad rigor definición y transparencia sino también el propio mensaje de acuerdo el propio respaldo con el que hoy esta cámara va a dotar a este proyecto del gobierno es un mensaje fuerte a los agentes socio económicos para que crean en el fondo para que se impliquen en el fondo y para que vean que este fondo no es una apuesta

txapuzak kudeaketan ez direla errepikatuko por eso pensamos que en marcha de este fondo con el marco de definición que se le da al acuerdo al que hemos llegado hoy es una apuesta o un punto de inflexión en la política

que así sea esperamos que sea la inauguración de una etapa en la que el gobierno asume compromisos más activos y más valientes en el liderazgo de la política saludamos la llegada de este fondo esperamos que sea un fondo que en el futuro se pueda llegar a reforzar esperamos además que no sea un hecho aislado el compromiso de este gobierno con la inversión pública en las empresas de este país

los países de nuestro entorno los países de referencia en el ámbito tienen gobiernos que actúan sin complejos en la promoción

la existencia de participaciones públicas en empresas industriales no es ninguna excepción es algo que funciona en países de nuestro entorno como francia y alemania y es algo que tenemos que fortalecer son países que

que invierten en ella que apoyan a sectores incluso cuando están en dificultades como el sector naval o el siderúrgico y esperamos como decía creación de este fondo suponga un cambio en la política de este gobierno hacia una visión más activa y hacia un liderazgo más desacomplejado

sin invadir las competencias que son propias de las empresas pero asumiendo sin complejos su propia función de liderar

con ambición marcándose retos e intentado que los agentes económicos y empresariales sigan marcada si esto es el inicio como decía de una política más proactiva en el camino encontrará a euskal herria bildu como ha encontrado con responsabilidad

si es el inicio de una nueva política volveremos a encontrarnos y por nuestra parte adelantamos que en una cuestión fundamental también para el futuro

vendremos con una propuesta en las próximas semanas una propuesta que ya está registrada para alcanzar el tres por ciento de inversión

el acuerdo que se ha generado hoy se pueda dar también en un aspecto tan vital como es este y a partir de entonces como decía donde haya proactividad y liderazgo público

son la principal herramienta que tiene la política industrial de este país y estos fondos de capital riesgo se han

con opacidad y de una forma incoherente a día de hoy el gobierno tiene un abanico de fondos en los cuales no se hace un análisis claro ni sobre las estrategias de inversión ni sobre las estrategias de desinversión no se sabe por qué se puede salir de una empresa como cel justo cuando va a quebrar

y luego general electric los devuelve y cierra no se sabe nada

hablo de los resultados económicos no de los financieros no hay una ligazón entre las pérdidas que tienen los fondos y el número de empresas que se han consolidado

real y no hay una evaluación y por lo tanto

y no hay una intención tampoco de regular cuestiones importantes como los comités de inversiones su composición y funcionamiento la transparencia que debe regir en las políticas públicas

cuál es la representación del gobierno y cuál es su misión en las empresas participadas y en la transacción a la que se ha llegado hoy y que se votará en el punto seis se dice claramente que el parlamento insta al gobierno vasco a hacer un seguimiento de la actividad de la empresa y garantizar que esta actividad se desarrolle de forma adecuada desde la perspectiva de los intereses generales y de la política industrial

esto no ha sido un principio que debería haber regido la política del gobierno en esta materia por qué se ha estado participando en alfa lan y se ha permitido que

por qué teniendo un treinta por ciento en la empresa xey no se sabía que iba a cerrar por qué se ha salido de cel justo cuando peor estaba la empresa

hay información que es oscura y es dudosa como la información que se nos ha trasladado sobre el fondo de doscientos cincuenta millónes de euros un fondo

un fondo que se dice que es público privado pero que todo el dinero es público no hay inversores privados

por su oportunidad cuando es público y notorio que se compran por

por lo tanto no podemos apoyar los puntos tres cuatro y cinco de la transacción a la que se ha llegado hasta que no se cumpla el punto número dos que dice que se presente en el parlamento la propuesta de fondo de inversión público privada que se ha anunciado en el primer semestre del año y que no se siga comprando acciones

cuando habla de información oscura y dudosa por supuesto tengo que referirme a la cartera de participaciones industriales de kutxabank el consejero azpiazu nos dice que es un banco privado y sin embargo las propietarias son tres fundaciones bancarias que están bajo el protectorado del gobierno vasco por lo tanto el gobierno vasco tiene una misión en esta cuestión y esta cartera de participaciones en enero de dos mil doce tenía cuatro mil seiscientos millónes y en diciembre de dos mil dieciséis

industriales de empresas no se sabe dónde han acabado algunas

están en las fundaciones están en empresas privadas no hay una información clara al respecto qué cartera le queda a día de hoy a kutxabank qué se va a hacer con esa cartera hay un plan de desinversiones

por lo tanto es fundamental llegar a una conclusión como la que se llega en el punto uno de la transacción y es

y pide que se busquen los modos más eficaces en colaboración con las instituciones para que estos capitales sigan en manos vascas pero a día de hoy actuamos como si no se supiera y sin embargo la consejera tapia ha estado con

seguramente el señor azpiazu la conoce también por qué no la conoce este parlamento por qué no la conoce la sociedad por qué no se sabe qué va a hacer kutxabank

es necesario enderezar el rumbo dubitativo y errático de la política industrial del gobierno vasco pero esto no es cosa de un día

son hechos son compromisos y por eso nuestro grupo hoy de esta transacción a la que ha llegado el grupo eh bildu con los grupos que apoyan al gobierno solo apoyaremos

crítica para ver si efectivamente esos tres puntos se cumplen el primero

clara a kutxabank y a las fundaciones que son sus propietarias para que el proceso de desinversión no signifique la pérdida de arraigo de las empresas vascas

un compromiso claro a kutxabank para que plantee su programa de desinversiones segundo que el gobierno vasco presente aquí en el parlamento en seis meses el diseño del fondo para el arraigo de empresas y que lo diseñe conjuntamente con los agentes socioeconómicos

utilice sus participaciones para garantizar que la actividad de las empresas participadas se desarrolle conforme a los intereses colectivos y no como sucede muchas veces conforme

que nada tienen que ver ni con los intereses de las plantillas ni con los intereses de este país por lo tanto como digo nuestro apoyo va a ser puntual y crítico a alguno de los puntos de esta transacción pero en ninguna manera se tiene que entender como un apoyo como un respaldo a la errática y dubitativa política
industrial que está siguiendo el gobierno en esta materia nada más muchas gracias eskerrik asko becerra jauna

gracias presidenta egun on estamos ante

bildu que parte de una interpelación del pasado día nueve de febrero basada según bildu en la falta de planificación coherente y continuada del gobierno vasco

y si bien la moción pretende ahora según el título

la realidad es que la parte resolutiva pues poco tiene que ver con esa pretensión desde mi humilde

puesto que plantea la preocupación sobre kutxabank y las desinversiones tiene cuatro puntos dedicados en exclusiva al fondo público privado de doscientos cincuenta millónes de euros que no

su moción un punto dedicado a las acciones a realizar por el gobierno vasco a través de su participación accionarial y los socialistas vascos en esta ocasión como ya lo hicimos hace unas semanas volvemos a reiterar nuestro compromiso de apoyo al gobierno vasco en la potenciación de la financiación de las pymes instándole a estructurar el fondo de inversión de doscientos cincuenta millónes

capacidad de desarrollo económico y voluntad de generación de empleo e instamos también a la revisión de los instrumentos financieros y de los programas

en la consolidación del empleo presente y futuro garantizando crédito a las pymes e impulsando

estratégicos y sostenibles y este acuerdo del pasado uno de febrero en esta cámara junto con el acuerdo de gobierno suscrito entre socialistas y nacionalistas vascos más el programa de gobierno para esta legislatura y el programa marco para el empleo y la reactivación económica y también el plan industria dos mil diecisiete dos mil veinte

de actuación y en definitiva de una planificación política concretamente del sector

y cuáles son sus componentes para el periodo en el que nos encontramos hasta el año dos mil veinte y estos son los elementos en los que los socialistas basamos nuestra opinión contraria a la manifestada en su momento por bildu tanto en su interpelación como en la comisión de desarrollo económico e infraestructuras el pasado seis de febrero

instaba la improvisación del gobierno vasco respecto a las políticas públicas sobre la industria vasca sobre sus instrumentos financieros de apoyo

y los socialistas vascos no compartimos de ninguna de las maneras la expresión de falta de planificación podrá no compartirse y no apoyarse

y sus instrumentos de financiación pero los socialistas no asumimos que no haya planificación ni en la política industrial ni en los instrumentos financieros que la apoyan que la impulsan o que la incentivan el plan industria dos mil diecisiete dos mil veinte planteaba

de un fondo público privado y decía la consejera de desarrollo económico e infraestructuras el pasado seis de febrero algo que los socialistas formando parte de este gobierno también compartimos y es que se está llevando a cabo la reordenación y modificación en parte de los instrumentos financieros

y por eso porque hay una nueva situación económica nos ha permitido poder afrontar nuevas situaciones y poder confluir en una mejora de la situación económica a nivel general y también por parte del gobierno vasco respecto a la legislatura anterior los socialistas vascos sí creemos que las políticas públicas respecto a la industria vasca

de esa planificación se comentaba días pasados que la unión europea consideraba

tenía la consideración de que estaban bien planificados y bien pensados y una planificación fruto de una trayectoria en el tiempo continuada da estabilidad

el consejo económico y social vasco ha apreciado en la política del gobierno vasco

esas políticas públicas bien definidas planificadas y bien desarrolladas contribuyen sin duda al objetivo de mejorar el sector económico

no son por tanto ni improvisadas ni ocurrencias aisladas propuestas al albur de no sé qué intereses puntuales

obedecen a una estrategia y responden a las necesidades que se han ido presentando

y responden también a un análisis profundo de cuáles son los instrumentos de financiación

que se puedan poner sobre la mesa para apoyar y acompañar a nuestras empresas

lo que pretende es garantizar por una parte el crecimiento de nuestras empresas y el arraigo de las mismas está pensado para empresas con potencialidad tecnológica

y ya lo dijo también la consejera la reordenación de los instrumentos financieros se establece por el gobierno por dos premisas la de oportunidad y la de necesidad oportunidad porque estamos en una nueva legislatura con nuevos planes en marcha y una nueva situación o coyuntura económica diferente a la de la anterior legislatura

los instrumentos las herramientas financieras deben adaptarse a las nuevas circunstancias y por eso el departamento de desarrollo económico e infraestructuras

tienen un amplio abanico de instrumentos que se ajustan a las diferentes necesidades por eso es también importante revisar en profundidad

los instrumentos que tenemos de diferentes fondos para cubrir precisamente esos diferentes nichos de actuación y detectar aquellos en los que no se está participando

por eso los socialistas valoramos positivamente que el debate sobre la financiación y la inversión pública de las empresas del sector industrial de euskadi encuentre hoy

un par de semanas en esta cámara en el que nos posicionamos políticamente respecto a las desinversiones de kutxabank que ya las anunció en el dos mil dieciséis y que está llevando a cabo para que las mismas en ningún caso

porque entendemos que es un elemento importante a tener en cuenta en el ámbito económico de euskadi y en su sector

en que en el fondo público privado se presente en el primer semestre de este año algo que la consejera también ya anunció el pasado seis de febrero y se nos informó de la situación

de las pretensiones del gobierno respecto a los socios por tanto un compendio de información que la consejera ya estableció en aquella ocasión y que hoy ha encontrado acomodo adaptación en una enmienda de consenso y de acuerdo con euskal herria bildu que como digo del acuerdo lo celebro pero poco tiene que ver con el título ese de la moción de planificación de los instrumentos o de la financiación de las empresas vascas

alderantziz esan nahi du mundu guztiak garrantzia ematen diola desde el momento en que el gobierno anunció

todos los grupos parlamentarios emitieron opinión sobre el mismo opiniones que arreciaron cuando tal fondo se concretó más en el plan de industrialización debatido y aprobado en octubre del pasado año tal plan recoge varias resoluciones sobre el famoso fondo y ya hemos mantenido entre otros el debate sobre si se debe subsumir en otros fondos preexistentes o si como definitivamente ha quedado aclarado debe ser un fondo nuevo

por un lado en la transacción que hoy hemos presentado hemos pactado que el gobierno nos explique cuando esté finalizado y en una comisión parlamentaria en qué consiste definitivamente el fondo quiénes son sus socios y cómo se conforma aunque en la última comparecencia de la consejera

comentando incluso que ya han contactado con alguna epsv y alguna entidad financiera que de manera preliminar ya apuntan buena disposición

se está trabajando en serio y más pronto que tarde conoceremos su estructuración en esta cámara por otro lado se solicita al gobierno algo que también parece lógico y es que el nuevo

en el plan de industrialización nunca se le ha pasado por la cabeza al gobierno otra cosa que el interés público el interés de país el construir país eso sí

si queremos que tal fondo funcione sirva para lo que se ha creado y tal fondo le acompañen socios privados como el fondo propuesto nos hemos puesto de acuerdo para pedirle al gobierno que una vez cumpla el objetivo de los doscientos cincuenta millónes de euros previstos en el plan de industrialización no se pare ahí

esta propuesta sí nos parece muy importante y es ilustrativa pues y esto hay que destacarlo también estamos de acuerdo en que los fondos de inversión son

y que también lo es la colaboración entre el dinero público y el privado este apartado de esta transacción tiene la relevancia de apoyar la política del gobierno

y que en la medida que le sea posible profundice en esa senda también es cierto que con la aparición de este nuevo fondo se va a necesitar una profunda reflexión

y por eso los grupos firmantes proponemos que el gobierno efectúe esa reflexión lo cual por cierto ya se debatió durante el plan de industrialización y poco después también lo comentó la consejera arantxa tapia el día que compareció para explicarnos la entrada

hay que hacerlo sin apriorismos pero hay que repensar si la cantidad de instrumentos de que dispone el gobierno son suficientes son excesivos

o si hay alguno sin cubrir en definitiva una reflexión para depurar sobrantes y cubrir huecos

inversión en diferentes empresas a través de sus distintos fondos lo haga efectuando un acompañamiento a los mismos y colaborando en ayudar a tomar las mejores decisiones eso el gobierno seguro que lo hace pero ahora lo seguirá haciendo sabiendo que el parlamento entiende que lo haga y se lo pide

que este camine por la senda del acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias

sé que esto tampoco es un cheque en blanco al gobierno y sé que todavía debatiremos desde nuestros diferentes puntos de vista

pero tengo la sensación de que hoy hemos dado un paso muy importante en el sentido de asentar bases pactadas

y básicamente del imprescindible trabajo de asentar en euskadi empresas tractoras que ayudarán a crear

y a crear nuevos puestos de trabajo y esto es empezar bien

es permitir continuar con el acuerdo en otros aspectos de esa política

lo que de común tenemos con un objetivo económico y político y dejar para otros debates lo que nos pueda diferenciar por eso

que ya vamos a tener muchos otros de desavenencias incluso hoy las hemos tenido como la de elkarrekin podemos aunque luego resulta que su propio grupo político en el congreso de los diputados en madrid le invite a la consejera arantxa tapia

y creo que no para criticarla sino para todo lo contrario en cualquier caso aprovecho cómo no para invitar a todos los grupos parlamentarios

continuemos avanzando no duden de nuestras ganas de hacer esfuerzos por el acuerdo no lo duden las empresas los trabajadores y el país

muchas gracias señora presidenta este es el tercer debate en tres meses

porque es el mismo debate que tuvimos en el plan de industria en el mes de octubre en el que ya se hablaba de esto es el mismo debate que tuvimos el pleno pasado el uno de febrero

hoy en la transacción figuran algunos puntos que ya aprobamos en aquel debate y quizás la novedad sea que en fin grupos que

o que hace quince días votaron o no apoyaron la enmienda de transacción

en este parlamento pues hoy parece

de lo cual nos alegramos que más gente y más grupos se incorporen a que eso le parezca bien

se le insta al gobierno a que traiga el plan al parlamento en el primer semestre que no dentro de seis meses el primer semestre acabaría en el mes de junio estamos casi a finales de febrero y por lo tanto no son seis meses sino que esperemos que el gobierno cumpla ese plazo y cuando nos presente ese fondo

o cómo no va a funcionar nosotros evidentemente ya hemos votado casi todo esto que se plantea aquí

ya lo hemos votado el otro día el uno de febrero y por lo tanto pues

en el primer punto de su transacción muestre al menos mi sorpresa y muestre mi sorpresa porque juntan ustedes los grupos que apoyan al gobierno

juntan ustedes kutxabank con las fundaciones y no son lo mismo y le instan a las fundaciones a hacer lo mismo que kutxabank y no es lo mismo

es decir las fundaciones no tienen ningún problema en tener participaciones de empresas industriales o no industriales y no tienen límite ninguno

cuando se crearon me acuerdo que el planteamiento era que era bueno que esas fundaciones además de tener acciones de kutxanbak tuvieran participaciones de otras empresas

digamos que los ingresos de esas fundaciones y les garantizaba mejor

parto de la base que no se va a cambiar ese primer párrafo de la transacción

a las fundaciones a que no desinviertan más allá de lo obligatorio cuando no tienen obligación de desinvertir de ningún tipo

es decir que las participaciones que tenía kutxabank fueran pasando a las fundaciones y el fondo que se creaba ahora

en esa reinversión por decirlo de alguna forma sino para invertir en otros activos y por eso me sorprende que en este primer punto se haya mezclado

fundaciones que controlan las cajas diciendo esas fundaciones que no les inviertan más allá de lo legalmente permitido cuando las fundaciones no tienen

legalmente y en fin espero que sea un error de los grupos que han firmado la transacción que sea

en fin estemos todos de acuerdo sigamos todos de acuerdo en que las propias fundaciones que controlan kutxabank puedan tener y puedan ser partícipes de participaciones en empresas industriales

o no vascas las que les parezca bien y evidentemente les den mayores beneficios para mantener su obra social y en todo lo demás repito evidentemente nosotros ya estábamos a favor del fondo que se revisen los demás instrumentos y ya se planteaba en el plan de industria y por lo tanto

para tranquilizar al señor damborenea en el acuerdo al que hemos llegado expresamente del proceso de desinversiones que está llevando la entidad bancaria kutxabank no estamos hablando de que las fundaciones bancarias estén inmersas en ningún proceso de desinversión y usted ha dicho y tiene razón una cosa es kutxabank y otra cosa las fundaciones bancarias

las fundaciones bancarias son las dueñas de kutxabank y por tanto

sobre las cosas que haga o deje de hacer kutxabank y por tanto la apelación a las fundaciones bancarias no es tanto a que no desinviertan lo que no han manifestado intención de desinvertir sino que en calidad de propietarias de kutxabank se cercioren de que efectivamente el proceso de desinversión sea el mínimo exigible por la legalidad europea y además

de comunicación con las instituciones vascas para que en ese proceso no terminemos perdiendo el control sobre el capital de las empresas de las que se retire kutxabank yo creo que por tanto la cosa está bastante clara ha habido algunos intentos de minusvalorar

lo que aquí se dice ya estaba dicho en otras ocasiones pero aquí se está poniendo por primera vez

de un acuerdo parlamentario a cosas que hasta ahora no se habían hecho empezando por el principio

es la primera vez que con esta solemnidad y en este marco a kutxabank se le pide que haga este proceso con

se están señalando yo tengo también dudas sobre la posición de algunos grupos parlamentarios en el caso de elkarrekin podemos yo no sé si están a favor de que se constituya este fondo

porque se pide claridad y aquí efectivamente pedimos claridad se pide transparencia y en este acuerdo se pide transparencia se pide que se cuente con los agentes sociales y efectivamente aquí se cuenta

ampliar en los doscientos cincuenta millónes y yo desde una óptica de izquierdas no entiendo cuál puede ser la razón

que no haga inversiones públicas en empresas industriales de hecho me atrevería a decir que es un poco ir a contracorriente

el que un gobierno precisamente en lugar de apostar por la privatización

de la legalidad más evidente entre a tomar parte en empresas industriales para garantizar su arraigo con el país es decir con una funcionalidad de servicio público y además para garantizar que la gestión de esas empresas se haga de acuerdo a unos parámetros de interés general yo no entiendo

a este planteamiento o por qué se busca limitar la cantidad de este fondo o no se apoya la posibilidad de ampliarlo porque eso no nos exime o no nos obliga a dejar de criticar la política industrial de este gobierno

en numerosas ocasiones y solo en referencia al tema que estamos tratando hoy con relación

la primera proposición no de ley que debatimos esta cámara a lo largo de la interpelación y durante la comparecencia

que considere que sean necesarios criticar pero mi función y yo creo que la función de los grupos políticos

desde el apriorismo criticar porque sí sino es criticar aquello con lo que no se está de acuerdo y si el gobierno ha puesto encima de la mesa un fondo

podemos como hemos hecho hasta el momento criticar las formas podemos criticar la indefinición

cosas que ya hemos criticado sobradamente a lo largo del tiempo pero cuando se presenta la oportunidad de además de criticar tomar parte en la corrección de aquellos aspectos que se critican entonces yo creo que lo que no tiene sentido es

propósito de corregir si en el futuro nos encontrábamos con que el acuerdo que hoy se ha firmado no se cumple en alguno de sus aspectos efectivamente ahí volveríamos a sacar el látigo de la crítica pero si entendemos que hemos contribuido a que este fondo

que es garantizar el interés general yo creo que hemos conseguido un logro importante y además como se ha mencionado anteriormente yo cuando venimos

prefiero subrayar las virtudes de ese acuerdo y subrayar los puntos de encuentro entre los partidos que hemos llegado a ese acuerdo porque creo que es la forma más positiva y constructiva de hacer las cosas realmente aquí muchas veces discrepamos a veces con

hay que ponerlo en valor eso no significa efectivamente

sigue presentando las carencias que a nuestro entender ha presentado hasta ahora

que debamos pero lo que respeta a este fondo hay un marco de entendimiento

para su presentación pública veremos si aquellos aspectos que no están recogidos en este acuerdo y sobre los

se reabrirá el debate pero ya sobre una propuesta concreta que cuantifique los fondos que identifique a los inversores

las formas jurídicas que se le va a dar y sobre todo eso que no aparece en este acuerdo

que se manda al país y a la sociedad de que este fondo cuenta con amplio respaldo

sino que responde a una política de país de que este gobierno y esta administración crea
apuesta e invierte en su industria eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

yo señor casanova sí comparto el espíritu que le ha movido a usted a presentar esta moción cien por ciento efectivamente como
como coalición de izquierdas no puedo estar en contra de que un gobierno invierta en empresas que pueden o bien estar en dificultades que de esto no se habla nada o bien puedan necesitar el arraigo estoy completamente de acuerdo y también puedo estar de acuerdo en que se cree un fondo específico

pero a priori no estoy en contra efectivamente nuestro grupo cuando llegue el diseño definitivo de ese fondo se pronunciará pero es que ahora mismo no tenemos ese diseño

lo ha dejado resumido perfectamente el señor tellería él ha dicho esta transacción

que por ahí va bien que por ahí va bien lo ha dicho el señor tellería y yo no está de acuerdo con eso el gobierno no va bien el gobierno tiene una política en materia de fondos específicamente que es incoherente y es errática y es incoherente y esta transacción incurre en una doble incoherencia además por un lado

de que hay que crear este fondo sin apriorismos y sin embargo en el punto tres ustedes dicen ya hablan definitivamente de incorporar socios privados con lo cual un grupo de izquierdas no tiene por qué necesariamente estar de acuerdo y en el punto cuarto dice que se puede ampliar su importe si todavía no sabemos si vamos a gastar lo que hay

que ha ayudado a cuatro empresas en la teoría sí pero si solo ha ayudado a cuatro empresas lo primero que habrá que analizar es

y el punto cinco dice crear el fondo y después hacer una reflexión sobre los que ya hay no no si nuestro grupo dice que es al revés primero hacer una reflexión sobre lo que ya hay

por eso no apoyamos en los puntos tres cuatro y cinco no porque el espíritu de su moción no sea loable que sí lo es

de hecho los puntos que sí vamos a aprobar son los puntos que contienen tres compromisos claros para el gobierno compromisos que el gobierno está obligado a partir de hoy a partir de hoy y en eso coincido con usted a cumplir

el día veintidós de febrero de dos mil dieciocho usted pactó no se arrepienta ahora y se lo dirán hasta el dos mil veinticinco seguramente nuestro grupo no va a hacer eso

pedir que los tres compromisos que vamos a apoyar se cumplan y son tres compromisos claros uno pedir a las fundaciones bancarias que por favor presenten aquí el plan

que tiene kutxabank a día de hoy para saber si esas empresas en las que se va a desinvertir van a seguir arraigadas en euskadi o no el segundo punto claramente que se presente en seis meses el diseño definitivo del nuevo fondo y efectivamente cuando se presente ese diseño si estamos de acuerdo como grupo lo apoyaremos sin ninguna duda porque como usted dice

es un fondo bueno para el país y en tercer lugar claramente que el gobierno haga algo que no ha hecho hasta ahora que es que con las participaciones que ya tiene se implique de las empresas para que esas empresas cumplan con su objetivo no solamente empresarial sino con el objetivo que tienen para el país y ese es nuestro compromiso por eso no vamos a hacer una oposición radical de este acuerdo de transacción pero evidentemente sí va a ser un apoyo crítico

que son razonables nada más gracias eskerrik asko becerra jauna

presidenta los socialistas vascos celebramos el acuerdo al que hemos podido llegar hoy porque entendemos

a la necesidad de la inversión pública en empresas industriales y en la interpelación que efectuó bildu en su momento y que motivó esta moción decía el señor casanova queremos saber qué pretende hacer realmente el gobierno en este ámbito estratégico queremos saber qué plazos prevé para ello queremos saber qué dimensión se quiere otorgar a este fondo qué caracterización cuándo entrará en vigor y pensamos que la sociedad tiene derecho a saberlo

político y eso se logra con el acuerdo de hoy todos escuchamos en comisión la posición del gobierno vasco

que las participaciones industriales en inversiones en empresas dedicadas a emprendizaje eran sesenta con un importe invertido de más de veintiuno millónes de euros

de euros invertidos en los fondos públicos como este de sustapen de basque de lanpar

está pensada y trabajada y se ha elaborado con el análisis correspondiente en el comité de inversiones y se han tomado participaciones en sectores desde la aeronáutica

o cualquier otro sector y este trabajo inversor pretende continuarse con este fondo público privado de doscientos cincuenta millónes de euros sin límite pero también nos decía la consejera ojala

va a ser un reto bueno pues si puede ser más mejor que mejor y eso también se consigue a través de este acuerdo

debe tener una continuidad en el tiempo y los instrumentos de financiación que la acompañan la impulsa y la incentivan deben tener también

esto no es obstáculo para que esos instrumentos puedan revisarse deban reordenarse en base a las modificaciones también de las necesidades que vayan surgiendo y que se vayan terminando es lo que se ha venido haciendo ahora es lo que también se establece en el plan de industrialización dos mil diecisiete dos mil veinte

si la financiación está bien planificada como también se ha reconocido

de organismos a nivel europeo internacional lo que queda es ser conscientes de que hay que evaluar esos instrumentos y conocer la deriva que van tomando si se adaptan o no a las necesidades que se intenta cubrir y si no se adaptasen reordenarlos revisarlos y rectificar que para eso

de esos instrumentos financieros que nos permitan favorecer y afianzar la competitividad de las empresas y hoy hemos intentado con este acuerdo dar un paso más en el entendimiento hacia un acuerdo político respecto a actuaciones que deben darse en materia industrial y que entendemos que profundizar aquel acuerdo que hace dos semanas adoptamos también

primero ratificar lo que ha dicho el señor casanova sobre las fundaciones las fundaciones se apela y si uno ve el original

se habla de las fundaciones como propietarias de kutxabank se habla de las fundaciones no le décimos a las fundaciones que desinviertan todo lo contario que no es así otra cosa es que la transacción pues desaparece ese trozo pero se apela a las fundaciones por esa razón sin más no es y en cualquier caso

me recalifica de derechas mire en este tema

y los pactos se llegan porque cada uno cede el problema es cuando por el postureo por el qué dirán uno no quiere estar con el otro y sobre sutilezas se levantan muros vale y entonces el esfuerzo que hay que hacer de la traducción de lluis llach de cincuentaestaca estirem per aquí

cada vez es más grande y usted se pone en una posición y recoloca a los demás en tal que se requiere mucho esfuerzo en este caso con eh bildu hemos hecho esfuerzo

nos unen cosas independientemente de posturas políticas que vaya usted a saber

nos ha unido la posibilidad de avanzar en construir herramientas que construyan país eso es lo que nos ha unido y yo vengo aquí a decir que eso está bien y que

es hacer aquí el postureo de yo soy de aquí y usted de allá levantar el muro pero luego en madrid que aquí no se enteran

eso es lo que no se puede hacer en cualquier caso yo insistiré en que el acuerdo es bueno y que este acuerdo debería de ser algo que nos permita avanzar en otros ámbitos de la política industrial y que ni nos vamos a poner nosotros en una derecha ni en el centro ni en el medio pensionismo ni a ustedes les vamos a colocar en la izquierda con la idea de construir país nos van a tener

pero estará conmigo que las fundaciones además de propietarias son fundaciones son instituciones y tienen su propia capacidad para actuar y en este caso

el parlamento vasco tiene más capacidad de instar a las fundaciones que al propio kutxabank como banco y segundo

le doy la importancia de que un grupo como el suyo señor casanova se incorpore al acuerdo tal

y el uno de febrero pasado votamos además revisar los demás instrumentos financieros

es que estamos reiterando y repitiendo debates y votaciones en el mismo periodo de sesiones y evidentemente no es culpa suya ni mía será culpa de quien en fin

cada quince días votando lo mismo en cualquier caso valoramos muy positivamente que ustedes

con lo que nosotros ya venimos votando desde el mes de octubre nada más y muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna esan bezala

señor lehendakari señorías presento esta moción consecuencia de la interpelación que presentamos el día dos de febrero al futuro de ikusmer el observatorio de la distribución comercial de euskadi tal

se decía en el inicio de su creación allá en el dos mil seis en esta cámara porque esta iniciativa fue impulsada desde esta cámara

ágil información actualizada sobre la evolución del sector comercial vasco es verdad que ha pasado mucho tiempo no voy a repetir el recorrido de este observatorio que ya lo hice en la interpelación pero la realidad es que hoy ikusmer el observatorio

o no no sabemos el señor consejero hizo mención a cuestiones técnicas que no se ajustaban a lo inicialmente propuesto pero que también reconocía

para que la secretaría técnica de este observatorio con la tutela de la dirección de comercio de cada gobierno porque han sido varios los gobiernos que han estado

de este observatorio decía que la dirección de comercio y la asistencia técnica del departamento adscrita al concurso del observatorio

y coordinando sus trabajos a través de reuniones mensuales con planes anuales y ahí están los resultados resultados reconocidos por el sector bien valorados por el sector reconocidos por otras comunidades autónomas ha sido un modelo en otras comunidades autónomas

sus estudios y sus trabajos hacía referencia el señor consejero que la creación de un nuevo departamento de turismo y comercio y consumo en tanto que tiene

más en el ámbito del turismo probablemente es obligatorio crear un órgano estadístico para todo el departamento para turismo comercio y consumo

a hacer un órgano de estadístico específico para el departamento y esto

replantearse el observatorio turístico de euskadi claro uno va al decreto de estructura del departamento y efectivamente en la dirección de servicios verdad pues está una de las funciones

es la dirección de la actividad estadística del departamento y del órgano estadístico específico pero también es verdad que uno va a la dirección

la de tutelar el observatorio de la distribución comercial y en el punto dos dice que se adscribe a la dirección del comercio la comisión de grandes establecimientos comerciales la comisión consultiva de comercio y el observatorio de distribución comercial

entonces en aquel momento el departamento tenía muy claro que iba hacer órgano de estadística y que mantenía

no sabemos qué ha pasado desde entonces que nos puede parecer oportuno esa distribución

más bien como les conté ha sido un tránsito el del año dos mil diecisiete complejo para este observatorio complejo porque se incorporaron tarde

complejo porque primero les dijeron que iban a ser adscritos nuevamente a las cámaras de comercio

tenidos en cuenta y que se iba a retomar su actividad

nos decía el señor consejero que claro en vez de seguir con la inercia que había que es lo que está en el decreto de estructuras nada más que aparta o hace un órgano de estadístico para todo el departamento pero el observatorio

y en esta situación su criterio su criterio

en la elaboración de los trabajos del plan estratégico y del plan director del comercio lo que abrimos es una

y yo aquí estoy ya perpleja porque hablaremos en su día del plan estratégico del departamento y del plan

pero lo que aquí nos dijeron el martes el sector del comercio es que ni han participado en este plan

a una reunión a una reunión donde había un comerciante y treinta y nueve personas que

está recogido sí está recogido no se preocupe señora

esto es la realidad pero es que algo me dice que no ha habido relación porque

el sector en la elaboración de los trabajos del plan estratégico el sector le ha dicho esto el sector desconocía lo que está haciendo el gobierno lo dijo desconoce perfectamente el plan director de comercio no es un plan suyo no lo asumen como suyo una maqueta vale para el comercio de aquí vale para el comercio de cualquier comunidad autónoma incluso puede ir a otros países de la unión europea perfectamente es un plan maqueta

no está personalizado ni se siente ese plan como propio del sector del comercio de la comunidad autónoma del país vasco

de eso y es que fíjese que aprobaron este plan el veintiséis de diciembre y el martes no lo conocían oiga les han llamado el miércoles les vamos a presentar fíjese qué detalle

terminaba diciendo las funciones siguen en vigor no hemos decidido digamos

no sabemos si lo vamos a eliminar o no pero creo absolutamente necesario y desde luego lo haremos

una reflexión en profundidad sobre la necesidad y sobre la utilidad de este órgano no sé si se refiere al observatorio del comercio o si se refiere al órgano estadístico porque intercala y mezcla y entonces la llama órgano estadístico a un todo para luego diferenciar

me quedo con la estructura que está en el decreto o con qué me quedo

decreto o no vale vale o no vale la verdad es que si en el decreto de estructuras están perfectamente diferenciados la dirección de servicios

en el órgano estadístico y la dirección de comercio va a ser

adjudica este órgano el observatorio de distribución comercial y va a ser el responsable de la gestión de ese observatorio qué ha pasado desde

este decreto de estructura hasta hoy qué ha pasado ha habido una corriente un mal aire luna llena qué ha pasado porque realmente parece que en su momento tenían las ideas claras

estamos como les decía tenemos este observatorio en el limbo y la verdad es que no sabemos cuál es la causa porque no se ha justificado la causa la causa era hacer un órgano estadístico propio ya está en el decreto de estructura

el observatorio de distribución comercial qué ha pasado en este ínterin nos lo cuenten nosotros hemos presentado una moción que es amplia porque queremos que recoja

observatorio el trabajo que se ha hecho durante estos años y por eso en el primer punto decirnos que el parlamento vasco reconoce que los servicios

de la mera generación u obtención de datos estadísticos gestionando un amplio depósito de conocimientos en materia de comercio recopilando información generada por otras

públicas o privadas produciendo y gestionando conocimientos propios en materia de comercio a través del análisis de la información detectada realizando encuestas de situación

propios y diseñando instrumentos de observación sectorial y espacial de la comunidad autónoma vasca además de difundir y divulgar el conocimiento en materia de comercio a través de actividades programadas y de ahí

de estas características en el segundo punto el parlamento vasco insta al gobierno vasco a reactivar a la mayor brevedad el servicio de la secretaría técnica del observatorio de distribución

diversos agentes que componen el entramado del sector comercial vasco

las federaciones de comercio agencias de desarrollo local oficinas técnicas de comercio etcétera igual que los propios comercios usuarios de este servicio en el tercer punto el parlamento vasco insta al gobierno

que está recogido en el plan director dos mil diecisiete dos mil veinte un programa de desarrollo del conocimiento para el sector de distribución en el que poder enclavar

porque está en la estructura del departamento y debería de figurar y si no

el servicio de las secretaría técnica del observatorio en los últimos años y por último en el cuarto punto décimos que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que

comparezca anualmente ante la comisión de comercio del parlamento vasco

en la comunidad autónoma vasca presentar las actividades que hayan venido desarrollando durante en apoyo del comercio vasco y su plan de actuación para los siguientes doce meses es decir tener una realidad de la actividad que este observatorio

porque es que no lo han cambiado por lo tanto dónde estamos

desde el grupo socialista y nacionalistas vascos han presentado una enmienda que

pájaros y flores o sea vale bien sí son objetivos que pueda hacer el observatorio

les falta algo se creen el decreto vale el decreto o modifican el decreto porque igual tenían que poner aquí un punto se modifica el decreto

estamos totalmente de acuerdo porque el punto

de eh bildu dice el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que adopte medidas para evitar la precariedad laboral de las trabajadoras

y busque la estabilidad del grupo de trabajo para que sean respetados sus derechos como trabajadores y trabajadoras y se logre un óptimo aprovechamiento de su conocimiento

yo en la moción pero lo ha hecho mucho mejor mucho más claro

nosotros votaremos a favor de esta enmienda de adición y en la enmienda de supresión también podemos eliminar ese párrafo porque efectivamente redunda o

señorías nuestro objetivo es que se mantenga esta herramienta que si hay que hacer modificaciones dentro de la herramienta del observatorio

de la distribución comercial se puedan hacer que se puedan adaptar que tenga que tener otro sistema de trabajo

pero nos parece una herramienta que ha sido válida y hay inercias

y las inercias no es destruir lo que hay la inercia será modificar mejorarla ser más útil para el sector

cabe una cosa y la contraria pero yo me quedo con el decreto de estructura que es lo que hoy tenemos

estamos hablando sobre cuáles deben ser los mecanismos de recopilación y tratamiento de la información en el ámbito del sector

y voy a empezar contando una anécdota hace unos meses en una

se presentaba a sí misma como una empresa especialista en la monetarización del último tramo de la cadena de valor del dato

complejo no me acuerdo el nombre la empresa me pasa como aquel que pedía ácido acetilsalicílico porque se olvidaba el nombre de la aspirina me acuerdo de lo largo y no de lo corto porque creo que esta definición

y del tipo de economía en la que estamos viviendo una economía en que los datos cuentan la información cuenta los datos tienen cadena de valor y parece que como

se aprovecha todo ya dijo hace mucho tiempo la sabiduría popular que información es poder y hemos llegado a un punto

como la sociedad de la información si la información siempre ha sido relevante

es constante el cambio no es una opción ni algo que suceda de forma periódica sino que el cambio es el nuevo paradigma y por tanto resulta importante tener bien afinada la brújula para detectar las tendencias de ese cambio

saber adaptarse y para ello dotar o estar dotado óptico tanto con carácter retrospectivo como prospectivo saber lo que ha pasado lo que está pasando y lo que puede pasar y es más probable que pase

de con qué instrumentos vamos a contar para la obtención

la gestión y la óptima utilización de la información vital para el futuro del sector del comercio

de dilema si fuera un combate de boxeo lo podríamos presentar de la siguiente manera tenemos dos opciones

un instrumento doble que consta de un aparato de recogida de información y de un órgano amplio de procesamiento y de análisis de esa información para convertirla en útil para el sector del comercio tiene diez años de experiencia y ha obtenido hasta el momento unos resultados óptimos valorados así tanto por personas cercanas al sector del comercio como por otros agentes de nuestro país y fuera de nuestro país

del gobierno que a día de hoy se resume fácil la oferta del gobierno es nada por un lado ikusmer y por otro lado nada porque el gobierno ha dicho que tiene que reflexionar

una parte de ikusmer el foro el observatorio estaba en el limbo llevaba sin convocarse durante años seguía subsistiendo la secretaría técnica y haciendo su trabajo el gobierno dice que tiene que reflexionar y por tanto dice que hay que parar

el gobierno pretende que se pare el mundo que no sucedan cosas que no haya necesidades de información que no funcione ikusmer ni su secretaría técnica

el que se para es el gobierno el que está parado reflexionando sin hacer nada es el gobierno mientras tanto el mundo sigue y las necesidades del sector del comercio están ahí haciéndose cada vez más críticas y más agudas esta propuesta que nos plantea el gobierno de sustituir ikusmer por nada mientras se lo piensan es una especie de salto mortal

al que agarrarse por lo tanto es garantía de un trompazo

es una auténtica chapuza poner en cuarentena o mejor dicho desmantelar lo que existe para no sustituirlo por nada hasta que se nos ocurra

ala ez baina gaur egun hori ez da existitzen existitzen da cierre porque el gobierno está pensando y cuando hablamos de cierre

técnica estamos hablando de mandar a casa a los trabajadores y trabajadoras y a parar su trabajo y su producción

gehiagorekin baloratzeko baita ere politika publikoen inpaktuan ikusmer no es un chiringuito no es un sitio donde se meta a la gente a dedo a cobrar grandes sueldazos

y pocos indios y una funcionalidad dudosa es exactamente todo lo contrario es pequeño es eficiente y es independiente y además es barato el

a la hora de valorar el trabajo de ikusmer diciendo que se estaba consiguiendo hacer más con menos indudablemente y eso lo tenemos claro ikusmer como todo en esta vida

pero no es prescindible hasta que se presente una alternativa que lo mejore y esa alternativa a día de hoy no existe

en la respuesta del consejero a la interpelación del partido popular y lo podemos volver a comprobar en la enmienda que nos han presentado los grupos que sustentan al gobierno y mire que cuando el señor consejero empezó su interpelación diciendo que en treinta segundos

pero evidentemente ni en treinta segundos ni en un cuarto de hora fue capaz de decir realmente qué es lo que quiere hacer con ikusmer porque probablemente no lo sabe lo que sí sabe es que se quiere

que han mantenido en unas condiciones absolutamente indecentes desde un punto de vista laboral y personal en unas condiciones indecentes y a través de un trabajo ímprobo y de una gran dedicación

un instrumento que ha prestado un valioso servicio al sector del comercio y a esta comunidad por tanto zerbait hobea baduzue ekarri eta eztabaidatuko dugu

miren decía el consejero de turismo comercio y consumo el pasado veinticinco de enero de dos mil diecisiete

en comisión explicando las líneas estratégicas de su departamento que el cuarto eje fundamental planteado en el asunto del comercio aunque no le viene mal tampoco al turismo es el referido a los datos y a la información y uno de los elementos que desde luego tiene posibilidades de mejora y lo estoy leyendo es la situación de los datos de que disponemos para analizar la situación del comercio en este caso pero también del turismo y su evolución sin buena información sin datos es difícil tomar decisiones y por lo tanto este es un espacio importante a considerar el de los datos y la información el mundo además en el momento actual

y necesitamos poner en marcha iniciativas para acelerar la digitalización en términos de producción de datos del comercio es necesario reconsiderar la producción y recopilación de datos sobre el sector la que utilizamos habitualmente para ayudar efectivamente a instituciones y al sector a tomar decisiones en la actualidad sigo leyendo nos encontramos con discontinuidades datos que se siguen durante un periodo y luego se interrumpen y encontramos una combinación confusa de datos producidos con diferentes metodologías o de distintas fuentes y también nos encontramos

de los indicadores al análisis de la situación actual del comercio si décimos que el comercio tiene que innovarse porque estamos en otro momento etcétera en ocasiones con los datos lo que acaba pasando es una cierta dictadura de un modelo viejo de análisis de la realidad este ámbito de los datos es transversal en el departamento y es necesario desarrollar formas efectivas de recopilación

de sistematización de lo que hay de análisis crítico de lo que hay para ver si algunas cosas han dejado de tener sentido y podemos plantearnos otras maneras de medir o recurrir a otras fuentes y también es importante en esta revolución de los datos buscar la manera de fusionar distintas fuentes de datos

que es en realidad el futuro este es un eje importante el de los datos un eje prioritario en el departamento en el diseño de políticas o para la orientación y dirección del esfuerzo

las mejores decisiones esto se decía el veinticinco de enero de dos mil diecisiete como una línea estratégica del departamento de turismo comercio y consumo y ahora vamos con ikusmer el observatorio de la distribución comercial de euskadi

en los cuatro párrafos de su moción reconózcase la labor de la secretaría técnica de ikusmer reactívese dicha secretaría técnica que finalizó su actividad señor casanova

la secretaría técnica acabó sus funciones acabó su contrato el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete

a la misma persona que lo ha venido llevando hasta ahora y que comparezca además en el parlamento y los socialistas vascos décimos que no a esta propuesta y voy a explicarme

situaciones anómalas con relación a ikusmer a día de hoy

y el problema de inicio se genera porque se crea por el departamento pensando en tener un órgano propio que es lo que dice

que se tenga un órgano propio con recursos humanos y materiales propios

a día de hoy se señalaba en el dos mil siete pero también en la modificación del decreto dos mil doce no desaparece la disposición final primera

un observatorio que no cuenta con recursos humanos propios porque se saca a concesión porque el año dos mil siete por circunstancias que entonces tenía el gobierno

a esos gastos de recursos humanos y por lo tanto convenía con las cámaras de comercio y aquellas cámaras de comercio proponen

en el año dos mil siete pero la oficina de control económico viene a decir en el año dos mil diez no señores o señoras del gobierno no pueden ustedes hacer por un convenio con las cámaras establecer a una persona en el observatorio ikusmer qué ocurre

y de ahí aparecen las licitaciones en el año dos mil once a partir de entonces se hacen las licitaciones públicas se saca a concurso público

ahora resulta que están de acuerdo con que se saque a contratación

es decir una gestión indirecta un tema que por decreto ya venía pero por circunstancias del gobierno que yo no estoy en esas a criticar no se pudo llevar a cabo con los recursos humanos propios

en el dos mil siete hoy estamos en el año dos mil dieciocho y como digo con uno de los ejes estratégicos por parte

comercio y consumo y como les decía el contrato finalizó el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete no se ha prorrogado no se ha renovado hoy no funciona técnica de acuerdo no funciona no tiene contrato y esta situación que nos trae al día de hoy es decir que no estamos

que lleva los asuntos del tema del turismo también se le ha encargado un cuadro de mando para el tema

que nadie se alarme hay datos se está trabajando la información se están haciendo y se harán los informes mensuales es decir que el comercio y además el propio departamento cuenta y contará con información en este ínterin hasta que se cree el órgano estadístico específico para que no haya malas interpretaciones

haberla la habrá pero la secretaria técnica no funciona porque no tiene y por lo tanto no puede funcionar hasta ahí lo que decía el consejero y que aquí se intenta manipular de alguna manera es que

hombre consejeros consejeras todos los que hemos estado en la gestión pública lo que menos queremos son líos oiga señora lópez de ocariz lo que menos queremos son líos en la gestión pero lógicamente cuando uno tiene una responsabilidad y asume una responsabilidad

está el tema de los datos está anunciando en enero del dos mil diecisiete qué es lo que pretende hacer es decir que a esto le va a dar una vuelta

en el periodo este que pasa así entre reflexiones no reflexiones pues ocurre que en el año dos mil diecisiete desde que se genera el decreto de estructuras del departamento hasta que empieza a trabajar la secretaria técnica con la contratación que se adjudicó provisionalmente en diciembre noviembre diciembre del año dieciséis ocurre que hay seis meses de inactividad de la secretaria técnica no funciona sabe usted por qué metidos en una serie de recursos en la licitación por lo tanto no hay secretaria técnica no se prorroga la secretaria técnica hay seis meses de inacción de la secretaria técnica hasta que en junio del año dos mil diecisiete es decir

es cuando empieza a funcionar la secretaria técnica hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete qué ha ocurrido en ese ínterin de inacción de recursos entre las empresas licitadoras

oiga es que ni formal ni informalmente ni oficial ni extraoficialmente

ni por parte de ningún parlamentario parlamentaria de esta cámara ni por parte de nadie de nadie nadie ha pensado por qué no estaban produciéndose

hasta julio del año dos mil diecisiete nadie así que pongamos las cosas en sus justos términos y no pretendamos alarmar decía usted reconozcamos la labor

que tenían adjudicada es que han cobrado es que yo no entiendo qué

porque alguien cumpla con el cometido para el que ha sido contratado ni más ni menos

lugar decía usted claro

porque alternativa había ya le dijo el consejero

un órgano estadístico específico claro que la hemos presentado

es lograr un observatorio como dios manda pero no uno que no ha progresado

no no no que a usted le haya venido mal la enmienda porque tiene un planteamiento claro que tiene un planteamiento

la interpelación del consejero verá cómo decía el consejero falta un informe al órgano estadístico específico le falta un informe el de la agencia vasca de estadística por lo demás y en cuanto se tenga ese informe se pone en marcha pero usted no usted dice que

y nosotros y en tercer lugar decía usted es que están no sé puede destruir una herramienta pero que oiga que no se trata de destruir se trata de que se ha acabado un contrato

de turismo comercio y consumo tienen perfecto derecho a decir cómo quieren organizarse internamente y cómo consideran qué es mejor y hacer un planteamiento como el que hicieron

tener un observatorio para el comercio de hoy

del año dos mil siete eso es lo que se ha pretendido con esta enmienda y lo que me extraña por parte de bildu es que entre a un trapo con una enmienda

diciendo que se suma que adiciona una propuesta cuando en esa propuesta ustedes dicen estamos por la externalización del servicio

oiga y además del cumplimiento de la normativa laboral que conlleva toda contratación pública en la cual se supone que hay unas condiciones salariales porque la contratación sale con un precio me quiere usted decir cómo establecemos una estabilidad laboral en un contrato

por el que se regulan los órganos estadísticos y específicos de los departamentos del gobierno

como si fuesen una ocurrencia de alguien en un momento determinado pero no están regulados por un decreto que desarrolla esta primera ley del ochenta y seis de la que hablaba

en el año noventa y tres en este decreto donde se regulan los órganos estadísticos específicos de los departamentos del gobierno se dice cómo tienen que actuar se dice

cómo están configurados orgánicamente se dice cómo se suministra la información en esos órganos estadísticos

y se dice también en la disposición adicional primera qué ocurre ante la inexistencia de estos órganos específicos estadísticos de los departamentos

será requisito indispensable que los mismos dispongan de un órgano estadístico específico por tanto estamos ante una necesidad de tener un órgano estadístico específico en un departamento que además es de nueva creación en esta legislatura aglutinando

de otros departamentos por tanto llego a ese punto llego a ese punto al que también había llegado

por el que se establece la estructura orgánica y funcional del departamento de turismo comercio y consumo pues bien en este decreto que es de once de abril de dos mil diecisiete efectivamente se adscriben los órganos colegiados

comerciales comisión consultiva de comercio interesante podemos hacer un paralelismo entre esta comisión consultiva de comercio y el pleno del observatorio y la distribución comercial y pensar si hay algún tipo de paralelismo e incluso de duplicidad

el observatorio de distribución comercial conformado por el pleno vuelvo a decir bastante coincidente con

y la secretaría técnica que no son unas personas concretas es un órgano de ese observatorio de distribución comercial y también la mesa de turismo de euskadi eso son los órganos pero es que todos ellos están creados por decreto

a partir de ahí el departamento empieza a trabajar y entonces

que supongo que iremos viendo pero es que además también ha dicho la señora lópez de ocariz que la dirección comercio es la que tutela el observatorio de distribución comercial bien

de estructura del departamento que es en la que se dice que

órgano estadístico específico mientras no se apruebe el decreto de creación del órgano estadístico específico del departamento turismo comercio y consumo se hace referencia

el que se creó con ocasión del departamento de industria turismo comercio en el año dos mil seis es decir

se asume la transitoriedad de este ámbito en tanto se crea y efectivamente en la interpelación el señor consejero nos dijo

y la estadística sea coherente sea fiable

todos los estándares estadísticos necesarios como decía están haciendo ese decreto de creación del órgano estadístico y está a falta del informe de la mesa

del eustat efectivamente bien toda esta arquitectura normativa que

yo creo que está muy bien armada y que nos permite afrontar los tiempos que vienen de una manera coherente

que yo no excluyo están dentro de lo que se ha venido a llamar el código de buenas prácticas de las estadísticas europeas esto todo está armado

en un entramaje que creo que es importante poner de manifiesto es cierto también

como bien ha explicado las señora corcuera que en un momento dado la

el convenio con las cámaras de comercio y por eso se saca por concurso se saca por concurso no la secretaría técnica se sacan las labores que debe hacer esa secretaría técnica a lo largo del tiempo pero efectivamente si

un órgano específico estadístico del departamento pues conviene tener en cuenta

que parece que vendrá en breve

por tanto nosotros hemos presentado una enmienda en la que lo que venimos a decir

el gobierno instamos al departamento de turismo comercio y consumo a que desarrolle ese órgano estadístico específico para la necesaria centralización y coordinación de las operaciones estadísticas a que elaboren un diagnóstico y análisis de las fuentes de información

pero todo ello en marcado en todo este entramaje normativo institucional que ya tenemos y que creo que es válido y que por eso hay que poner en valor y lo que hay que hacer es

es la situación y futuro de ikusmer el observatorio de la distribución comercial de euskadi que tiene como objetivo evaluar y analizar la dinámica comercial de la comunidad

como ya ha explicado la señora lópez de ocariz y el resto de parlamentarias que me han precedido ikusmer se crea en el año dos mil siete como iniciativa de la dirección de comercio del gobierno vasco

que sea de interés real para los diferentes agentes del sector en donde entrarían desde la propia administración pública el gobierno vasco ayuntamientos así como agencias de desarrollo local oficinas técnicas de comercio y asociaciones de comerciantes por otro lado su actividad se centra en el seguimiento y monitorización de la situación del sector recopilando datos noticias y estudios

organizando jornadas y eventos de interés y utilizando como principal herramienta de comunicación la página web donde se recoge toda esta información y se difunde todo este conocimiento tan imprescindible

seguimiento del sistema comercial nos facilita realizar una fotografía más exacta como es el comercio en euskadi y lo que es más importante conocer cómo son los consumidores vascos ikusmer

e innovación social del gobierno vasco para los años dos mil seis dos mil nueve

se plantean tres ejes para el trabajo cooperación excelencia empresarial y gestión del conocimiento es precisamente en torno a este último objetivo donde se fragua el observatorio del comercio

el objetivo principal de ikusmer es analizar la evolución del sector para poder emprender acciones que nos posibiliten llegar a estos objetivos

y la captación de tendencias existentes a nivel estatal y europeo mediante la producción compilación y evaluación de información estadística dirigidas

la mejora de la eficacia de las políticas institucionales y la satisfacción de los consumidores la visión a su vez

en la compilación de información sobre el sector de la distribución comercial en todos sus ámbitos

marcada por el rigor la transparencia y profesionalidad de técnicos cercanos a la realidad comercial y expertos relacionados en la citada materia dentro de la actividad de ikusmer podemos diferenciar entre el trabajo de carácter estructural y el trabajo coyuntural el primero se sustenta en el barómetro de comercio y el barómetro de la demanda así como en los grupos de trabajo

asimismo el trabajo de carácter coyuntural es aquel que surge de la necesidad inmediata

de igual forma ikusmer es el nuevo responsable de la elaboración semestral del informe del comercio vasco uno de estos estudios es el barómetro del comercio que analiza la realidad existente cuatrimestralmente desde el punto de vista de los comerciantes

pertenecen al comercio minorista y unos trescientos al comercio mayorista

como pueden ser la antigüedad del sector el nivel de formación de los comerciantes la superficie de ventas

y las diversas campañas de rebajas el barómetro de la demanda es la otra cara de la moneda es decir

a través del índice de confianza del consumidor vasco el ico

de los consumidores preguntando y consultando a través de una serie de entrevistas y cuestionarios

que residen en euskadi permitiendo así conocer los cambios y tendencias en los hábitos de consumo de la ciudadanía vasca

han sido valoradas positivamente y reconocida su utilidad

en estos diez años hace un par de días sin ir más lejos las diferentes asociaciones de comerciantes de euskadi que comparecieron en la comisión de turismo comercio y consumo manifestaron su satisfacción con el observatorio como herramienta de utilidad para detectar las diferentes debilidades

en dos mil doce el gobierno vasco modificó el decreto que regulaba el observatorio del comercio vasco con el fin de dotarle de un funcionamiento más ágil los cambios se manifestaron en su estructura interna

de treinta a veinticuatro sin que por ello se restase representatividad a los sectores implicados además se trazaba un plan de trabajo

se repasaban los datos y actuaciones del sector en clave de pasado sino que como principal novedad se iban a analizar en qué dirección se movía

entre otras cuestiones se buscaba analizar la percepción de la ciudadanía de las campañas de fomento y apoyo al comercio además de elaborar un informe específico sobre las necesidades del propio sector en materia de financiación así como su valoración de las ayudas públicas hasta el dos mil diez ikusmer estaba gestionado a través de un convenio privado

ese año el modelo cambió al convocarse un concurso público con estas modificaciones ikurmer culminó un proceso de transformación en dos mil doce

convertirse en un referente como fuente de información para el sector comercial de euskadi según el propio gobierno vasco

apostó de forma decidida por este instrumento sin embargo ahora parecen haber cambiado de opinión repentinamente

de la web ikusmer se consolida como referente para la consulta de información sobre el sector de la distribución comercial en todos los ámbitos nos parece que los

son muchos como ya hemos relatado como para que la dirección de comercio el departamento de turismo consumo y comercio y el propio consejero el señor retortillo hayan decidido no incluirlo como herramienta de trabajo en el plan director de comercio dos mil diecisiete dos mil veinte

colectivos y asociaciones del sector es fundamental para considerar al observatorio de distribución comercial de euskadi como una herramienta de trabajo imprescindible para el futuro y evolución del comercio vasco

por la comunidad del sistema comercial vasco es valorada y es referente en otras comunidades y en el ámbito internacional en el pleno de ikusmer están representados

las asociaciones empresariales de comercio la asociación de las grandes empresas de distribución comercial la asociación de supermercados de euskadi las federaciones territoriales del comercio de euskadi o la confederación de asociaciones comerciantes hosteleros y empresas de servicios de euskadi a su vez también

las asociaciones de consumidores del país vasco los sindicatos el instituto vasco de la estadística las cámaras de comercio el tribunal vasco de defensa de la competencia el instituto vasco de la competitividad

la agencia vasca de la innovación y las universidades vascas por todo esto vamos a votar a favor de las enmiendas presentadas por el grupo popular y por eh bildu

del observatorio que va más allá de la obtención y elaboración

por que se restablezca la actividad de ikusmer y que se incluya esta herramienta dentro del plan director de comercio dos mil diecisiete dos mil veinte respetando la estabilidad del grupo de trabajo

los derechos y las condiciones de las trabajadoras así como también vemos necesaria la comparecencia anual de la secretaría técnica en la comisión de turismo comercio y consumo

en los siguientes meses de esta manera no compartimos la necesidad de crear otro órgano estadísticos específico tal y como proponen en su enmienda

no entendemos por qué habiendo ya una herramienta referente que cuenta con el consenso de los diferentes agentes del sector como es ikusmer y cuyo rendimiento ha sido positivo y satisfactorio

deshacerse de él crear un organismo nuevo porque yo creo que no lo saben ni ustedes y nos preocupa qué razones se ocultan detrás de esta decisión que adolece de falta de transparencia

que precisamente al departamento de comercio no le sobran el sistema comercial vasco quiere seguir pudiendo contar con ikusmer y ustedes deciden en contra de todos

cuál es el objetivo real de este movimiento a qué intereses responde a nosotras todo esto nos huele bastante mal mila esker eskerrik asko